autoescuelas dando clase de castellano autoescuelas dando formación sobre limpieza autoescuelas formando sobre gestión de almacenes y mientras los que de verdad se dedican a hacer estas formaciones las epa centros públicos se encuentran vacías

vacíos la cuestión es por qué y esta es la realidad de la formación para el empleo en euskadi y no esto no es un chiste

en euskadi esa de la que este gobierno habla tanto pero cuida tan poco

que la propia señora artolazabal reconoció que no existe ni transparencia ni control sobre la formación para el empleo desde lanbide

para que impartan cursos pero no exigen a las entidades la justificación de los costes de esas acciones formativas una vez más dinero público

a control alguno y así lo reconoció literalmente la señora artolazabal en la interpelación que le realizamos dinero público en subvenciones

es gravísimo porque para este gobierno no es responsabilidad suya hacer seguimiento de los fondos públicos que emplea para la formación para el empleo por qué

y se lo voy a decir yo porque la formación para el empleo se ha convertido en un negocio un negocio

donde el personal formador y las personas usuarias son quienes sufren las consecuencias y qué pasa con los formadores y las formadoras para el empleo cuál es la situación de estas personas desamparo e invisibilización

por parte del gobierno vasco porque para este gobierno

no vaya a ser que se fastidie ese negocio también y pese a que la señora artolazabal nos dijo que era consciente de la importancia de la calidad que el personal formador tiene

de la información impartida casi medio año después de la interpelación usted y su gobierno no han tomado ninguna medida concreta para poner freno a este descontrol porque señora artolazabal no podrá decir que no ha tenido tiempo usted su departamento y su gobierno

no podrá usted decir que no ha podido ser el gobierno vasco quien tomase la iniciativa en este tema

tiempo ha tenido para hacerlo casi seis meses seis meses desde que la escuchamos reconocer este descontrol seis meses sin noticias de su departamento

pero si a la hora de la verdad no se pasa a la acción de nada sirven las buenas palabras señora artolazabal

al gobierno vasco a que de una vez por todas actúe por el reconocimiento del colectivo de formadores y formadoras para el empleo y trate de ofrecerles soluciones ya es hora de regular la situación de las personas formadoras para el empleo porque estas personas se merecen ese reconocimiento

porque este no reconocimiento es el responsable de que los formadores y las formadoras para el empleo no estén en una situación laboral digna porque este no reconocimiento es el responsable de ese despilfarro de dinero público y porque este no reconocimiento es el responsable

y hemos hecho un esfuerzo incorporando en nuestra propuesta de transacción enviada a los grupos

y lo hemos hecho porque somos conscientes de la necesidad de ensanchar lo máximo posible este acuerdo necesario y justo para ofrecer unas condiciones dignas

nos hemos encontrado por parte de los partidos que sustentan al gobierno un muro un auténtico muro sin voluntad alguna para tratar de llegar a un acuerdo

a lo mejor usted como la señora de la inacción perpetua es consciente de la importancia de las personas formadoras para el empleo a la hora de la verdad nada de nada miren porque esto tampoco es un chiste en la enmienda transaccional finalmente firmada con euskal herria bildu

la del pnv y la del pse en su totalidad repito en su totalidad respuesta del pnv no lo vemos y hoy a falta de dos horas para el punto y viendo que se avecinaba otra derrota para el gobierno tratando de llegar a acuerdos mientras vaciabais de contenido los puntos de la enmienda transaccionada

ustedes tenían claro desde un principio su voto negativo a dignificar las condiciones del colectivo de formadores y formadoras para el empleo pasase lo que pasase su voto iba a ser no pues no le dé más vueltas y díganlo bien claro les importa

la precarización y el no reconocimiento de los formadores y las formadoras para el empleo y hoy se está reafirmando creo que por tercer punto consecutivo que dentro de su auzolana queda mucha gente fuera pero ante vuestra

y este descontrol encima de la mesa y lo hacemos con soluciones y con miras a un futuro cercano soluciones que en un principio van a contar con el apoyo de euskal herria bildu

a los cuales les agradezco su disposición a acordar desde un principio porque hoy damos el primer paso para que esto cambie ante la negativa

y hoy una vez que este gobierno ha perdido de nuevo una votación en este parlamento su gobierno tiene que ser sincero y decir si va acatar este mandato que le hace la mayoría de representantes de la ciudadanía o no mójense

aipatzen dena la formación profesional para el empleo constituye uno de los instrumentos que contribuyen de manera decisiva a la inserción laboral en el mercado de trabajo a la mejora de la empleabilidad de personas trabajadoras lo recoge el decreto por el que se ordena la formación profesional para el empleo en euskadi

económico y social y es por eso un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social eso es lo que dice la página

en este sentido la lógica lleva a pensar que teniendo en cuenta la importancia que se le otorga y que todas le reconocemos a la formación para el empleo todas aspiraríamos a contar con un cuerpo de formadores y formadoras de alta calidad

un cuerpo de profesionales reconocidos profesionalmente y capaces de ofrecer resultados de aprendizaje a las personas que acceden a los procesos formativos

la existencia de un nuevo perfil profesional especializado sin embargo la realidad es que la formación en la comunidad autónoma vasca esconde muchas realidades esconde muchas realidades pero una de ellas es la de los y las profesionales que se dedican a la formación por el empleo y es la de la precariedad de sus condiciones laborales lan hauetan ari diren profesionalak

yo creo que es una realidad a tener muy en cuenta lo que estos profesionales de la

porque verdaderamente es un sector estratégico quizá una parte por lo menos una parte seguro que tiene otras aristas pero por lo menos una parte de este problema

las convocatorias en las que se marca el trabajo de estas profesionales por ejemplo la convocatoria del dos mil diecisiete de hobetuz salió

provisional llegó en julio y la definitiva en octubre muchas acciones formativas se pusieron en marcha en este marco por el mes de noviembre y finalizaron el treinta junio que era justo cuando íbamos

la de este año tiene fecha de veintisiete de junio se publicó exactamente el cinco de julio con una corrección de errores unos días más tarde pero bueno más o menos cuándo calculamos que se resolverá sobre el mes de octubre o así verdad con lo cual estamos un poquito en la misma situación que el año pasado en las que perdemos como

de posibilidad de impartir esa formación y eso nos deja con convocatorias de

le podríamos añadir lo que en este momento se está pagando por esos módulos que es diferente también si las como es lógico no si la formación va a dirigida a obtener certificados de profesionalidad o no pero lo que en este momento también se está pagando se paga por módulos por alumno y las cantidades tampoco es que sean demasiado

que se dedican a la formación mantener puestos fijos para las personas que imparten esta formación cómo se puede hacer para que estas personas tengan empleos estables son las propias convocatorias las que obligan a tener a optar por la flexibilidad de las contrataciones esto en hobetuz pero la situación

formativas para las personas desempleadas y podríamos desglosar pero la situación sería la misma y en esto tiene mucho que decir lanbide

como habíamos dicho inicialmente la formación para el empleo pero es verdad que lanbide tiene unas funciones muy importantes asignadas en este sentido lanbidek beregain hartzen ditu

lotura zuzena eta lotura estua lanbiderekin pero sobre todo la supervisión y el control de las acciones formativas corresponde también en gran medida lanbide

lanbide quien se encarga de certificar a los y las profesionales que cumplan los requisitos y después poder hacer las homologaciones pero parece que después hay un vacio

por eso para nosotros la iniciativa que hoy se plantea ante esta situación

ante esta situación que usted mismo comentaba en la que había cierto descontrol es muy importante lo que se estaba planteando hoy que no es otra cosa

qué es lo que está pasando qué es lo que pasa con esas convocatorias en qué marco están desarrollando estas personas esa formación esas actividades formativas en qué condiciones son contratadas bueno todo ese paquete que estábamos marcando en el primer punto que se pongan

que influyen directamente en la calidad de la formación que se está ofreciendo porque eso es innegable se puedan corregir y a partir de ahí podamos avanzar además

siguiendo esas recomendaciones que nos hacen desde europa a crear ese nuevo cuerpo de profesionales que se puedan dedicar a ello y que pueda servir también como reconocimiento a una tarea que se está desarrollando que estamos todas reconociendo que es estratégica y que tiene

una importancia vital en todos los que son los procesos de acceso al empleo de cohesión social de mantenimiento de un empleo de calidad y de todos estos elementos por eso nosotras vamos a apoyar

porque nos parece que es un tema a analizar que sabiendo que hay una situación que cuanto menos es poco deseable aunque no se pueda hablar a lo mejor de irregularidades sí que es una situación poco deseable que ningún gobierno que pretenda

se estén dando en el marco de las actuaciones que organiza pues tiene que afrontar tiene que afrontar este análisis tiene que ver qué es lo que está pasando analizando qué soluciones se pueden establecer y sobre todo bueno pues ver

y además las condiciones en las que desempeñen ese trabajo pueda ser de dignidad eskerrik asko

arratsalde on bueno pues tratamos hoy en el quinto punto del orden del día

julen en nombre del elkarrekin podemos registró en este parlamento todo tiene sus tiempos de tramitación no solamente las convocatorias de subvención se justifica la propuesta en la unión de dos conceptos el de

compartimos el objetivo como ya hemos dicho en numerosas ocasiones de la que creación del empleo pero no de cualquier empleo de un empleo de calidad y no nos cansaremos de repetirlo

este aspecto el de apostar por una creación de un empleo de calidad es el que diferencia el actual plan estratégico de empleo de otros planes anteriores por lo tanto yo creo que tenemos un punto de partida compartido que me atrevería a decir que podíamos haber

también es cierto que para transaccionar y para llegar a acuerdos no de cualquier manera porque lo importante no es llegar a un acuerdo para no perder una votación que parece que a usted le preocupa me interesa llegar a acuerdos con un contenido cierto real efectivo y lógico no por el simple hecho de perder o no una votación no se preocupe que en eso nosotros

mucha demagogia y mucha cuestión de aquí en adelante

concluir por esto que los actuales formadores para el empleo los que actualmente realizan estas tareas no están acreditados o reconocidos yo no lo puedo compartir y les digo esto

el grupo proponente recibió del departamento de empleo y políticas sociales el pasado mes de marzo en ella

en euskadi y los socialistas y espero que también usted confiamos en que todas estas personas son profesionales buenos profesionales

y que lo hacen desde la profesionalidad que han acreditado con compromiso con calidad y con el objetivo de formar eficazmente a los desempleados y trabajadores las condiciones que estos profesionales deben cumplir y usted lo sabe están debidamente reguladas a través o bien de reales decretos o en los programas formativos en función lógicamente de que hablemos de formación para obtener certificados de profesionalidad o no por tanto no podemos concluir que no estén regulados los requisitos que estos profesionales deben cumplir

formadores es más y usted lo sabe no hace ni un año que el gobierno de españa desarrolló a través del real decreto seiscientos noventa y cuatro barra dos mil diecisiete la ley treinta barra dos mil quince por la que se regula el sistema para la formación profesional para el empleo en el ámbito y en ella se establecen las condiciones para garantizar el derecho a la formación de los y las trabajadoras y se regulan aspectos como es el cálculo del coste de la formación que incorpora dentro de él el coste del personal docente ahora bien no fija importes y por qué pues seguramente porque la fijación de las condiciones laborales tales como el salario o la jornada

ni al congreso de los diputados ni a este parlamento sino que es una materia reservada por ley a la negociación colectiva entre los agentes sociales imagino

en otras ocasiones y que no pretenden sustituir a través de iniciativas parlamentarias las funciones que deben de tener y deben cumplir estos agentes seguramente no por ello a mí me ha extrañado que siendo este uno de los sectores que tiene en este momento convenio sectorial vigente como mínimo de ámbito estatal

o profesores de formación no reglada se solicite por los grupos que el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno vasco regule la situación del colectivo para asegurar que disponen de unas condiciones de trabajo dignas

porque yo no quiero intuir de su propuesta y usted me lo aclarará que considera que las condiciones que han sido pactadas por los sindicatos son indignas porque lo ha utilizado usted ahora en su primer turno considera que son unas condiciones indignas que la fijación que han hecho de que la jornada máxima anual sea de mil cuatrocientos cuarenta y seis horas

euros anuales para la categoría de profesor o que los complementos de dedicación o de desarrollo y capacitación profesional u otras de las cuestiones que vienen reguladas en el convenio

se activen todos los mecanismos existentes para su control y su exigencia pero no solamente en este sector y en cualquier otro sector en el que nos encontremos tampoco hemos llegado a comprender cuál es el objetivo de generar un cuerpo profesional ni qué es exactamente lo que se propone bajo esta denominación puesto que actualmente para acreditarse como formador se regulan diversas titulaciones que pueden acreditar la formación en función

un mínimo de experiencia también en función de los diversos certificados módulos o unidades formativas en el camino que recorremos los diferentes grupos señor bollain para poder llegar a amplios acuerdos y respaldar propuestas pues no hemos tenido el éxito que seguramente todos hubiesemos deseado

de la situación de la formación para el empleo pero se han obcecado en que dentro de ese diagnóstico las condiciones laborales

podíamos compartir esa realización del diagnóstico porque sí es cierto que tener un informe que nos diera elementos de juicio orientados fundamentalmente a evaluar la formación

supuestamente nos preocupa a todos de capacidad para el empleo y para obtenerlo

para nosotros era también un instrumento importante pero no creíamos que tuviera que estar centrado en cuestiones de condiciones laborales que no nos competen ni al parlamento ni al gobierno en esa redacción genérica usted no ha querido entrar y por tanto nosotros tampoco hemos podido estar

un muy difícil encaje pero la enmienda que nosotros de forma conjunta hemos presentado con el grupo nacionalista propone

que se generan en el mercado se actualizara ese diagnóstico

el tema de cómo es o sea cómo está nuestro sistema qué calidad tiene pues evaluemos esa calidad y comprobemos

de los requisitos legales establecidos tanto en cuanto a la capacitación de los formadores como de las condiciones laborales que están establecidas en el convenio que es de aplicación

pero en este momento no ha habido suerte para alcanzar ese acuerdo en cualquier caso pues seguiremos intentándolo

teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno debate sobre la proposición de ley de formación profesional del país vasco y la reforma de lanbide

y la pregunta que se formulaba la consejera era cómo iba a asegurar el gobierno vasco la calidad de la formación para el empleo a través de un cuerpo de formadores acreditado

onartu ez ziren zuzenketen bitartez además un pequeño detalle también una cosa es la ley que regula la formación profesional aprobada recientemente por esta cámara y otra distinta muy distinta

treinta barra dos mil quince que es la que regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que ha sido desarrollada en el año dos mil diecisiete como exponía la señora castelo

sus compañeros del congreso de los diputados puedan presentar alguna iniciativa al respecto a fin de conseguir lo que están proponiendo en el ámbito competente bestalde

que sinceramente no le vemos demasiado sentido por lo expuesto el discurso del señor bollain en la defensa de su moción se centró

en las condiciones laborales del personal formador

no es competente para establecer las condiciones laborales

cualquier trabajador o trabajadora podemos compartir con el grupo proponente la importancia de que los y las formadoras tengan unas buenas condiciones laborales así como del resto de trabajadores y trabajadoras pero no creemos desde luego que el modo de conseguirlo

en este pleno cada jueves es importante que les quede claro que existen diferentes centros que dan formación profesional para el empleo

concertados y privados en euskadi lanbide no tiene ni un centro propio de formación para el empleo así como

la red de centros públicos que dan formación para el empleo en euskadi están todos incluidos en los centros públicos dependientes del departamento

existen una diversidad de tipologías de centros que se dedican a la formación profesional para el empleo como dice la ley treinta que regula la formación profesional para el empleo la formación

y por autónomos que prestan servicios a los propios centros por requerir impartidores con un alto nivel de especialización lo cual a nuestro juicio imposibilita hablar de una única categoría y unas condiciones laborales únicas para este colectivo tan diverso y distinto

ámbito específico para ser tratados como bien saben ustedes dentro de la negociación colectiva está en manos

de la representación de los y las trabajadoras de los sindicatos y de la parte empresarial sentarse y acordar para obtener las mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras cada uno dentro de su sector o ámbito de trabajo o dentro de su categoría profesional hay centros que se rigen por el convenio de oficinas y despachos otro por el convenio de las ikastolas otros por el público de administración o por el de entidades del tercer sector

ezta las obligaciones básicas establecen en dicha normativa estatal que guarda coherencia también y como no podía ser de otra manera con la legislación europea es importante tener meridianamente claro que la formación para el empleo es reglada

en dicha normativa estatal y básica no tenemos competencias en euskadi para poderlo

la calidad del sistema de formación profesional para el empleo se garantiza mediante los siguientes instrumentos que ya le fueron expuestos en la contestación a la interpelación por la señora artolazabal que sí están dentro de las competencias propias del gobierno

es requisito de obligado cumplimiento para cualquier entidad de formación que desea acceder a las subvenciones estar inscrito previamente a las convocatorias en este registro de esta forma se garantiza que todas las entidades cuyo objeto social

reúnan una serie de requisitos en cuanto a instalaciones equipamientos y recursos humanos marcados en las especificaciones técnicas del catálogo de especialidades formativas el análisis del cumplimiento se hace mediante el examen documental y las visitas de comprobación personal de los centros

cuyo objeto es garantizar que la formación que se asocia a cada especialidad

garantizando unos estándares de calidad que permitan que las personas que cursan la formación de lanbide tengan derecho a la obtención de un título o en el caso de la formación

también se determinan las horas de formación que ha de tener una acción formativa

la comprobación de lanbide para dar de alta una especialidad formativa o reformar las existentes son relativas a garantizar que las mismas tienen un significado para el mercado laboral en términos de empleabilidad

para la cualificación de los y las trabajadoras en cuanto al fichero de docentes cualquier centro que quiera impartir formación profesional para el empleo ha de contratar

una plantilla de docentes que reúnan la titulación o experiencia profesional en las especificaciones técnicas descritas en las especialidades formativas se permite ambas asimismo existe un registro de la competencia que incluye el de los certificados de profesionalidad el sistema de formación profesional para el empleo consta con un segundo instrumento que incide en la calidad del mismo la prospección

y sindicatos que participan en el consejo de lanbide mediante una metodología de análisis prospectivo del mercado de trabajo y se define un diagnóstico de necesidades formativas que determinen la priorización de las especialidades formativas a programar en el año de forma

la empleabilidad de las personas este es un trabajo conjunto del observatorio del mercado de trabajo vasco y del servicio de formación por último

si hubiera alguna denuncia de los y las formadoras o se apreciara alguna infracción en las visitas que los técnicos de lanbide realizan a los centros de formación para el empleo se ponen en conocimiento de la inspección de trabajo la competente para dirimir sobre las mismas beraz eusko jaurlaritzak estatuko oinarrizko legedia aplikatzen du

muchas gracias señora presidenta señores consejeros señorías miembros de la cámara buenas tardes a todos

todos tenemos la idea cuando oímos hablar de estos cursos de formación

financiados desde la administración pública que no solamente financiados desde la administración pública porque la necesidad es grande

curiosamente a un colectivo de personas que lo que quieren es mejorar en el empleo que tienen unos por el puro afán natural muy humano de mejorar en sus condiciones de vida y otros

unas condiciones precarias en el empleo que tienen en ese momento sufren la precariedad en el empleo algo de lo que tanto hablamos últimamente en esta cámara

esos cursos están en las mismas condiciones de precariedad que quienes lo reciben eso es lo que he oído a las cuatro intervenciones primeras que había en la cámara y eso es lo que el señor bollain dejó claro en la presentación de la iniciativa es lo que la señora kortajarena también dejó claro en su enmienda y es lo que los grupos que

en la primera de las enmiendas que nos han traído porque solicitan que se mire se revise si efectivamente se cumple la legislación laboral vigente es decir si no se cumple es porque el trabajo se está llevando a cabo en condiciones

precariedad por lo tanto tenemos un problema encima de la mesa tenemos un problema muy serio y ante ese problema se presentan distintas soluciones por parte de los grupos nosotros no hemos enmendando porque entendíamos que la proposición

es necesario elaborar un informe es necesario conocer qué es lo que está ocurriendo de verdad en esos centros de formación es una amalgama muy amplia y ya se ha hablado aquí que hay centros privados hay centros públicos

otros están sujetos a otros otros no están sujetos a nada otros son autónomos

sus condiciones son muy diferentes pero lo lógico y lo normal es que si el problema está encima de la mesa está reconocido por todos los grupos de esta cámara habrá que buscar una solución y la solución tiene que ir más allá del simple cumplimiento de la legislación laboral vigente o de las condiciones de la homologación de los grupos que es lo que ha propuesto

en su primera enmienda nosotros estamos de acuerdo en que se haga ese diagnóstico ese análisis ese informe en un plazo lo más corto posible yo creo que somos muy generosos y parece ser que a la señora consejera le parece bien que se haga en el plazo de un año y se lo encargamos a usted lógicamente es el departamento de empleo y yo entiendo que es de donde sale la mayoría de ese dinero público dirigido a esas subvenciones de esos cursos y que deben ser ustedes quienes lo controlen porque además tiene en sus manos un instrumento que creo que es muy importante ya sé que están en pleno

pero precisamente lanbide es un instrumento que puede ayudarle a hacer a elaborar ese diagnóstico y volver a ser un instrumento útil no lo que es ahora en este momento que es una patata caliente que le ha caído dentro del departamento quizá vuelva a ser porque cuando se creó lanbide sí era útil

sirva también para intermediar en muchos contratos o para hacer estudios para el gobierno para ver las verdaderas necesidades del sector y poder utilizar esos datos ese es el punto primero del diagnóstico que pedimos nosotros que ese diagnóstico llegue muy lejos es cierto

que el problema de las condiciones laborales de los formadores

ver cuáles son las necesidades de los alumnos ver con qué calidad

que se cumpla la ley es algo importante en materia de legislación laboral que estén dados de alta en la seguridad social que estén

trabajando y no por lo que se les ofrece en esas empresas en condiciones

pero en algunas ocasiones se lo encargamos a usted y lógicamente también al departamento de educación puesto que los centros públicos de empleo dependen de su departamento es cierto que se lo podríamos

conseguir tener un objetivo más ágil y más rápido utilizando ese

en la opinión de lo que se ha oído esta tarde en esta cámara porque si uno sale a la calle y habla y pregunta a la gente por los cursos de formación de empleo

mucha gente los alumnos que han estado allí algunos tienen buenas opiniones

interesantes para la recolocación o para la búsqueda del primer empleo y si uno habla con los formadores nos encontramos con problemas todavía más graves a parte de los problemas de personal que tienen con las empresas de las que depende que son muy grandes aparte de eso te encuentras con otro problema y es que la gente asiste a esos cursos por el mero hecho de asistir

la práctica imposibilidad de llevar a cabo la labor para la que han sido contratados porque la gente no tiene ningún interés

que sean inviables conseguir los fines para los que esos cursos han sido pensados y bien dotados por las arcas públicas por eso nosotros vamos a apoyar el acuerdo de elkarrekin podemos y de bildu porque entendemos que hay muchos problemas entre esos cursos de formación para el empleo que una posible solución es esta a la que han llegado al acuerdo y nos preguntamos y de momento

los grupos que sustentan al gobierno viendo que hay un problema grave

que y de verdad le han dejado a usted señora consejera en muy mal lugar cuando le dicen que lo que tiene que hacer usted es comprobar que los centros de homologación cumplen los requisitos para los que fueron homologados y pensará que eso ya se hacía bueno pues los grupos que sustentan a su gobierno en la enmienda han dicho que hay que comprobarlo

de los grupos que apoyan al gobierno se supone que es información privilegiada pensarán que no se comprueba por lo tanto yo le insto a usted a lo que vaya haciendo antes de la elaboración del informe y ya que pidan

legislación laboral en empresas que reciben subvenciones públicas que lo exijan los grupos que apoyan al gobierno

las condiciones de comunicación con el grupo socialista y con el grupo nacionalistas vascos para ver qué escriben en las enmiendas

dinero público a alguien que no cumple las condiciones de las subvenciones y eso además de un problema para los cursos de formación y para quienes acuden a esos cursos de formación

retomando un poco el hilo del señor ruiz de arbulo que hacía referencia al punto cinco

de la enmienda realizada por nacionalistas vascos y socialistas vascos la señora arregi también ha dicho que se actualiza anualmente el diagnóstico de necesidades formativas entonces tampoco entiendo yo por qué también mete en este punto dentro de la enmienda cuando ya se está realizando verdad

me han dicho que no corresponde tratar ciertos asuntos de condiciones laborales en esta cámara y que no le ven sentido miren el sepe dice textualmente en una respuesta

que hicimos la determinación de las funciones y honorarios de los formadores en las diferentes comunidades autónomas corre a cargo de la autoridad laboral competente en cada una de ellas correspondiéndole al servicio público de empleo estatal establecer unos máximos para cada especialidad formativa refiriéndose

por lo tanto vemos cómo estos temas a tratar

sí merecen ser tratados en esta cámara y se pueden llevar

desde esta cámara me decía

que no tenían claro qué queríamos que no tenían claro qué queríamos por lo tanto yo no entiendo esa contra oferta de transacción

cuando recoge la transacción entera a la que hemos llegado a un acuerdo con

solo que vaciando el primer punto de la misma por lo tanto no sé por qué si no tienen claro qué es lo que pedimos nos mandan esa misma transacción solo que vaciando el primer punto

lo que querían cuando enmendaron nuestra primera moción porque no le veo ningún sentido a esa enmienda cuando su negativa desde un principio ha sido rotunda y luego decía la señora castelo perdón señora castelo vamos el noventa decía usted compartías el objetivo que compartía el objetivo resulta que el noventa por ciento de las intervenciones que tenemos conjuntas usted y yo comparte el objetivo de la iniciativa comparte el objetivo pero sin embargo con la correa que tiene de su socio de gobierno nunca llegamos a ponernos de acuerdo

que siempre sean temas económicos temas fiscales en ese sentido de condiciones y de unos diagnósticos para

cuestiones en las que estamos llegando y hemos llegado a acuerdos a nivel estatal pero sin embargo en esta cámara nunca podemos llegar a acuerdos quizá
quien falla es su socio de gobierno y no somos nosotros señora castelo eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

que no es competencia de los gobiernos regular las condiciones laborales de los profesionales ni las relaciones contractuales que tienen esos profesionales esos

con las entidades o las empresas que los contratan pero el marco el marco en el que se producen esos encargos a las entidades y a las empresas es determinante para después desarrollar las cosas también en condiciones y en eso sí que este gobierno tiene

de regular de controlar de establecer de manera eficiente sus convocatorias de subvenciones por ejemplo de establecer unas condiciones que verdaderamente permitan

que el desarrollo de esas funciones va a estar acorde al objetivo que se marca y que además va a permitir que las condiciones laborales de las personas que trabajan en esos cursos

egia esan si todo está establecido si todo está muy bien ordenado si todo está bien encuadrado

desempeñando bien sus funciones no entiendo lo que está pasando pero desde luego hay algo que no funciona cuando este tipo de situaciones

son frecuentes y desde luego dibujan una situación de precariedad que no creo que sea adecuada

en ninguna relación que pueda tener la administración en el desempeño de sus funciones

yo me pongo de acuerdo con muchos de sus compañeros de formación

no conseguimos llegar a tantos acuerdos pero le voy a recordar que alguna que otra vez incluso ha celebrado que usted y yo hayamos llegado dentro de las materias de su competencia

en fin tampoco hay que tener complejos llegamos al acuerdo cuando estamos orientados los dos en la misma línea pero hay veces que nos cuesta girar de todas formas

el tiempo pues se dicen cosas que es lo que se dicen porque la enmienda presentada por el grupo

o la estamos intencionadamente manipulando dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a actualizar anualmente el diagnóstico de necesidades formativas y a adaptar la oferta formativa a las necesidades que se hayan detectado en este sentido y creo que con esto

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a comprobar la calidad de los cursos de formación que se imparten así como el cumplimiento por parte de los centros de los requisitos necesarios para la implantación de los cursos

además de comprobar que cumplen con la normativa laboral vigente aquí no se está diciendo que hay incumplimientos

que no se hace aquí se está diciendo que la dirección correcta es esta el gobierno lo hace y el parlamento cree que tiene que seguir haciéndolo y que no tiene que bajar la guardia en ello en fin si eso no les parece a ustedes suficiente pues perfecto

sí hay determinada normativa que se puede regular

y yo estoy de acuerdo en hacer un diagnóstico del marco y así lo hemos dicho pero ustedes han querido para el diagnóstico pusiéramos la foto ya querían una foto concreta y condiciones laborales

por mucho que ustedes quieran no nos corresponde establecer condiciones laborales y ustedes hablaban de salario

o por necesidad de la propia empresa igual la empresa tiene que concentrar formación en prevención de riesgos laborales en diez horas y hace un curso específico a la empresa claro es que estamos pensando

pero bueno a veces así son las cosas por tanto yo creo que lo que hace se hace en buena dirección y debe de continuar

nos tiene que supervisar el gobierno cuando enmendamos somos grupos parlamentarios tenemos autonomía tenemos criterio tenemos política no sé si los demás

algún grupo de esta cámara que no ha enmendado pero va apoyar

lo que os hubiera dado la gana porque hubiese apoyado seguro sí que sí

elkarrekin podemos que tiene una cierta persistencia en sus ideas ya lo había traído para la tramitación de la ley de formación profesional ya lo había traído si el señor bollain está insistiendo

en aquella fecha en la que en fin no nos marcaban los dictados desde otros sitios ni habían pasado otras cosas pues había otro grupo que no lo veía y le rechazaron su enmienda y usted se acordará como me acuerdo yo pues mire usted hoy va a tener más suerte porque los astros se han unido no porque compartan con usted desde la izquierda ninguno de estos posicionamiento sino por el tema de tumbar por tumbar

y creo en lo que estoy haciendo eskerrik asko castelo

señor bollain hoy no tocaba interpelación esa

intervención para defender su postura la mitad han sido preguntas al gobierno que ya le contestó en su día creo que

que creía que para que hubiera una formación de calidad era importante

compartimos se lo hemos dicho pero en realidad se ha dedicado todo el tiempo a meterse con el gobierno con la inacción con este grupo parlamentario con el partido socialista con que si no vamos de la mano con que si nos tienen que enmendar la plana desde el gobierno

que no que hoy no venía a cuento para nada

es siempre de dos partes nunca es de una ni evidentemente solo y yo no se preocupe porque

no pasa nada si perdemos votaciones cuando creemos que lo que estamos defendiendo

lo correcto yo sabía perfectamente lo que iba a hacer el señor ruiz de arbulo y el partido popular desde ayer pero cuando se presenta una enmienda a la totalidad normalmente es porque no se está de acuerdo con lo que se ha presentado se presenta una enmienda a la totalidad porque no se comparte

por lo tanto no entiendo lo que nos ha estado intentando achacar

un acuerdo creo que podría ser y entonces ha sido cuando he dicho bueno pues me voy hacer un esfuerzo

pero he dicho lo voy a hacer porque creo que si en el fondo estamos de acuerdo podemos intentarlo usted ha dicho que no

cuando lo que le estábamos quitando era todo el tema de las relaciones laborales sueldos jornadas horarios que creemos que en absoluto son competencia de este parlamento compartíamos el hecho del diagnosis

el tercero de los puntos que se instara al gobierno del estado porque era el que tenía las competencias al respecto creo que un acuerdo es cosa de dos entonces hablemos de todo en su conjunto cuando le digo el tema

que desde luego no son competencia de este parlamento y además es que en mucho casos si nos metiéramos

y las trabajadoras en cuanto al tema de la inacción perpetua también que achacaba pues le voy a decir que en la nueva convocatoria de subvenciones lanbide valora dentro de sus competencias que estas sí son valora va a dar veinte puntos sobre cien

teniendo en cuenta la plantilla media de trabajadores que tienen en plantilla porque como he leído antes podían trabajar también con trabajadores autónomos

el número de contratos indefinidos que tienen que consta esa entidad

tienen en plantilla todas estas cosas se van a tener en cuenta y van a valer veinte puntos sobre cien por tanto inacción del gobierno no es cierta y aquí se lo demuestro con hechos como usted le suele gustar decir y el tema

lo contemplábamos también la señora castelo ha hecho referencia a lo mismo pero yo creo que es importante

entendemos y así es que lanbide está realizando su labor

y manifestó el día de la interpelación pues

a encargar a una entidad que vaya a dar la formación para el empleo revisa todas las que esté de acuerdo a la normativa y también se regulan y se mirarán que se estén cumpliendo las condiciones laborales como no podía ser de otra forma porque si no no podrían dar ninguna subvención

se ve que no nos sienta muy bien contrastar ideas justo después de comer y la cosa

que es necesario hacer un diagnóstico que hay un problema encima de la mesa y por eso independientemente de quién vote qué o quién utiliza un argumento u otro lo que hay que atender es al mandato de esta cámara que le pide a usted señora artolazabal a usted no a la consejera de educación que no está ni a la de trabajo para que el tema se pueda hacer se lo pedimos a usted

haga ese estudio vea cuál es el origen de esos problemas

no hay más que hablar con los ciudadanos con los que están asistiendo a los cursos con los que imparten los cursos

y sabemos que ese problema está encima de la mesa por qué no se ha querido llegar a ese acuerdo hoy no lo sé lo desconozco no quiero pensar mal no me gusta

no voy a seguir por esa línea le puedo asegurar que la voluntad de nuestro grupo es que se haga el diagnóstico que se utilice y si yo me quedan tres coma treinta y siete claro la señora castelo dirá que como no he preparado el debate me sobra tiempo y me voy a tener que inventar alguna cosa no me he inventado ninguna señora castelo a mí no me gusta

se lo he dicho alguna vez a la señora presidenta recuerde a los parlamentarios que no son tiempos obligatorios que son tiempos máximos y a veces en dos minutos o en tres se puede decir todo lo que otros utilizan quince veinte media hora o dos horas

absolutamente nada repásese por favor la enmienda que presentaron y repásese otras muchas enmiendas que su grupo y el otro grupo que apoya al gobierno presentan a multitud de iniciativas en las que siempre se habla seguir haciendo continuar haciendo mejorar lo que ya se hace y en este caso dice claramente que se haga es un imperativo que se compruebe la calidad y que se compruebe el cumplimiento de la normativa y de las condiciones de homologación cuando yo le digo a alguien que haga una cosa no es para que continúe haciéndolo porque entonces le diría sigue así

es porque no lo está haciendo o fallan las relaciones de comunicación entre los grupos del gobierno y ustedes o el gobierno tiene un problema porque ese dinero público no se sabe dónde está yendo e igual esa es una de las causas
por las que no se ha llegado a un acuerdo hoy muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señora presidenta buenas tardes señores consejeros señorías bueno todos

durante todos estos últimos meses semanas los informativos los medios de comunicación y hemos constatado la situación que desde estos meses vive

el gobierno nicaragüense como otros gobiernos de sus características lleva muy mal

y que proteste por la situación terrible de pobreza por la situación de deterioro social ya no existen vestigios de democracia

en este momento que nicaragua es uno de los países más pobres del mundo

una interesante visita de estudiantes y profesores nicaragüenses en el pasado veintiocho de junio nos recordó

la brutal situación de represión y violencia y amenaza que vive el país

de represión a campesinos a estudiantes a trabajadores de represión a mujeres de represión a colectivos de lgtbi nos hablaron

de corrupción generalizada en las más altas instancias asesinatos habituales constantes en protestas en manifestaciones

álvaro conrado de quince años estudiante del colegio jesuita loyola que fue asesinado por paramilitares en una manifestación

falta en ese país absoluta de institucionalidad

a ellos y a todo ello que nos contaban estos jóvenes estudiantes y profesores nicaragüenses se unen las amenazas a

las torpes fundamentalmente actuaciones gubernamentales

hay que leer detenidamente la declaración de este año del parlamento europeo en relación con la descripción de estas cuestiones hablaban también y se habla y se constata

organización de estados americanos del cerco mediático que se ha instalado en el país prohibición a determinados medios a determinados periodistas de ejercer en libertad su profesión

estas cuestiones la expulsión del alto comisionado de naciones unidas

impedir hacer su trabajo para los derechos humanos en nicaragua hablan las fuentes también que huyen quinientos nicaragüenses cada día de ese país

cerca de seis millónes de habitantes además en esa información recientemente pudimos ver hace pocas semanas

el semanal que distribuyen algunos medios de comunicación

de otras zonas de españa y pudimos ver un reportaje descarnado en septiembre hace unas pocas semanas en ese reportaje

el mismo hablaban de más de cuatrocientos cuarenta muertos de setecientos desaparecidos

de cosas tan brutales como la quema de las viviendas con las familias dentro por no dejar a los paramilitares disparar desde esas casas a los estudiantes o a los manifestantes es decir no hay más que leer ese reportaje

bien con esto instituciones como el parlamento europeo la comisión europea

han expresado su profunda preocupación por la situación de vulneración de los derechos humanos en nicaragua y por el deterioro constante de la democracia de los derechos civiles políticos de los nicaragüenses han condenado todas estas instituciones y muchas más los crímenes

el malestar de los ciudadanos con respeto a los poderes políticos en nicaragua

a las primeras protestas en contra de la reforma del sistema de la seguridad social se han añadido nuevas cuestiones sobre el funcionamiento de la democracia de las instituciones y el estado de derecho

también debe incluir reformas políticas en el país en concreto una reforma del sistema electoral y posiblemente un calendario electoral acordado entre otras cuestiones como decía antes los medios de comunicación de fuera de nicaragua han informado

de los derechos humanos perpetradas por la actuación gubernamental y las organizaciones extremistas y paramilitares de apoyo al régimen gobernante sin embargo los medios de comunicación nicaragüenses no informan no pueden informar sobre lo que pasa en ese país

decíamos en la exposición de motivos de la iniciativa que son innumerables las declaraciones comunicados o pronunciamientos de distintas instituciones y gobiernos

del servicio europeo de acción exterior tenemos que reiterar

sobre la decisión del gobierno nicaragüense de dar por terminada la presencia de la misión de la oficina de alto comisionado para los derechos humanos de las naciones unidas recientemente

dura contundente pero realista y descriptiva del parlamento europeo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho es decir prácticamente cuando al poco de empezar las manifestaciones que en sus consideraciones describe una situación extrema

con el protagonismo violento de los agentes gubernamentales

y apellidos absolutamente clarificadora de los responsables de toda esta situación también tenemos que recordar y hay que recordar la declaración especial sobre la situación en la república de nicaragua del dieciséis de julio del dieciocho

costa rica ecuador guatemala honduras méxico panamá

también la organización de estados americanos oea condenó los actos de violencia en nicaragua llamó a participar

en una resolución aprobada por el consejo permanente el pasado dieciocho de julio esta es la situación es clara todos la hemos podido conocer hemos hablado en esta cámara muchas veces de países

que tienen situaciones complicadas hemos hablado muchas veces o algunas veces de venezuela hemos hablado aquí muchas veces de colombia y en este caso

vasca trabajando allá en organizaciones no gubernamentales o en intereses económicos sociales

también por esta situación y por los vínculos que desde luego tenemos como todo el mundo sabe y por eso presentamos esta proposición

que hemos acordado asumiendo desde luego las

enmiendas que hacía el grupo socialista enmiendas de adición que hacía el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos en relación con la situación de violencia en nicaragua

efectivamente el primero para condenar los hechos de violencia acaecidos en los últimos meses

trasmitir nuestras condolencias desde este parlamento a las familias de las víctimas y lamentar ese

exigir que ponga fin a toda represión y a las detenciones arbitrarias expresar la preocupación y rechazo por la reciente decisión

sobre el terreno eso es básico también que el parlamento vasco haga suyo los pronunciamientos de las instituciones de la unión europea como la resolución

de resoluciones o de comunicados en relación con esa situación efectivamente las dos enmiendas eran totalmente asumibles porque eran de sentido común trasmitir el apoyo al centro nicaragüense de derechos humanos y recordar su labor de denunciar documentar informar a la comunidad

y por último que el parlamento vasco denuncia la

y de su gobierno que auguran tiempos ciertamente duros y difíciles para la población de nicaragua esta es la iniciativa que sometemos a la consideración de la cámara y quiero recordar porque lo cierto es que seguir

que me ha servido más de referencia para muchas cuestiones que ha sido el país y alguna colaboración de algún periodista ha sido interesante recogerlo y seguirlo y verlo con realismo lo que pasaba

decía en un artículo titulado los progresistas y nicaragua qué decir o hacer

que se transforma en la sombra del dictador que derrocó pregunta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

digu nicaragua nos duele de una forma un tanto especial gran parte de la izquierda vasca española europea y americana creció con los anhelos que en su momento representó la revolución sandinista miles y miles y miles de internacionalistas estuvieron en nicaragua apoyando al pueblo de nicaragua en contra de la dictadura en contra también del imperio entre ellos

luchando contra el imperio de los estados unidos que intentaba aplastar un pequeño país un paisito centroamericano que anhelaba sueños de justicia y construir un país esperanzador para el resto de la región un país con justicia social un país

posible revertir décadas de dominación pero se perdieron las elecciones

dieciséis años después nuevamente

liberales nuevamente esperanza para el pueblo de nicaragua esperanzas renovadas

areagotu baitziren hala ere gobernu herritar eta progresistek aurrera egitea lortu zuten y estamos en un contexto geopolítico porque si no

de una década ganada en los últimos gobiernos democráticos progresistas y avanzados que ha tenido américa latina fuera de los designios

un contexto que está yendo hacia atrás pero que también están sabiendo resistir y

golpe permanente en venezuela vuelta atrás de los avances sociales en ecuador juicios farsa

desestabilización orquestada en centroamérica y con eso sí que no se han atrevido por tercera vez oyendo a nicaragua una

elaborada por obama y aprobada por trump que establece sanciones económicas a nicaragua y volvemos a decir no a sus gobernantes sino hasta el pueblo y no sé por qué hasta el dos mil diecisiete no se impuso esas sanciones a nicaragua quizás tiene que ver con un canal cuestionable luego hablaré de ello que ha decidido hacer junto a una empresa

allí canal cuestionable pero a qué jugamos con estas sanciones

horiek onartzen ditugu y no nos tiembla la voz

pero somos críticos desde la izquierda eta

leialak leialak herriarekin y quizás las críticas que hacemos no son algunas por lo menos las mismas que hacen ustedes

hacer al gobierno a la gestión de estos últimos años del gobierno de nicaragua pues precisamente son esas relaciones privilegiadas con la iglesia católica que ahora parece que

que es lo que ha imposibilitado cambiar la matriz económica de nicaragua o esa no legalización del aborto

económico o también nos cuestionamos la gestión del canal

mobilizazio legitimoa ospatu zen una reforma que no compartimos desde la izquierda no le he oído decir nada sobre eso señor barrio porque es lo mismo que ustedes hacían aquí en ese caso impuesto por el fmi aquí venían dictados por europa

y se producen uso totalmente desproporcionado de la fuerza por parte de la policía del gobierno de daniel

de represión de manifestaciones con fuego real que no es que no compartamos sino que rechazamos y condenamos rotundamente

pero también y creo que se les ha olvidado hay un sector de la oposición que no estoy hablando de toda la oposición que ha utilizado la violencia para atacar alcaldías

que se cifran en muertos en más de un centenar sumando esa cifra

desde que comenzó la crisis de nicaragua

somos críticos pero somos responsables somos críticos con todas y cada una de las muertes somos responsables con el futuro de nicaragua no hay muertos de primera ni muertos de segunda sean opositores o gente progubernamental o gente que pasaba por allí por eso presentamos esta enmienda una enmienda que lamenta profundamente la pérdida de vidas en nicaragua que condena

ha vivido el país y los que pueda vivir que instamos a las partes al gobierno y a la oposición a no recurrir a la violencia que se respete el derecho legítimo a la protesta y que el orden se mantenga de una forma normal gainera

y exigimos y acompañamos el diálogo nacional y la resolución pacífica de las controversias porque pensamos en nicaragua aquí y en todas partes que son la mejor de las salidas para solucionar

sufre nicaragua pensamos que nicaragua es un país libre que es un país soberano y por eso defendamos la libertad del pueblo de nicaragua al resolver

pacífica en diálogo nacional y sin ningún tipo de injerencia externa y pensaba acabar aquí pero creo que citar

a nicaragua y a cualquiera de las crisis que pueda estar viviendo

la oea luis almagro a la cabeza creo que usted señor barrio

imbécil a un expresidente del gobierno del estado español por intentar mediar y hacer de puente en la crisis de venezuela

se desacredita como institución si mantiene a un pirómano como luis almagro a la cabeza por tanto vuelvo a repetir el sentido

de nuestra enmienda llamado al diálogo respeto al diálogo respeto a la solución de las controversias por métodos pacíficos y respeto también a la soberanía de nicaragua y a lo que decidan los nicaragüenses y las nicaragüenses eskerrik asko

eskerrik asko arratsalde on escribir sobre nicaragua es tan doloroso y triste como indispensable leer

es tan doloroso y triste como indispensable escuchar sobre nicaragua es tan doloroso y triste

hablar sobre nicaragua es tan doloroso y triste como indispensable eta gaurkoan hemen tamalez

anitzetakoa emateko por ello a mi parecer

lo que necesita nicaragua es más bien una invitación a cuestionarnos a analizar y construir a partir de algunas preguntas que tenemos

después de este debate no basta con la recuperación descriptiva de los hechos es indispensable una caracterización de los hechos ocurridos para profundizar en un análisis crítico que permita una mejor comprensión de las tensiones y desafíos que ante los escenarios de disputa por cambios o continuidades en las correlaciones de fuerza queremos para nicaragua aquello que clama su pueblo

ari den honek hortik kanpora doa el conflicto que se vive en nicaragua se debe solucionar en nicaragua a través del dialogo social

que tiene sus propias instituciones legítimas cuestionables pero legítimas no es un país con soberanía limitada y por ende

el intento restaurador llega de la mano de una derecha internacional mucho más agresiva consciente de que las demandas de ganancia del gran capital se producen en un mundo más competitivo con otro actores globales fortalecidos

y en circunstancias en que su principal centro de poder estados unidos está operando de forma peligrosa

en virtud de que conoce su poderío global está en declive como se demostró

y más recientemente en guatemala estados unidos trata a los pequeños países centroamericanos como colonias de segundo orden

que la revolución sandinista significó la tercera derrota de estado unidos nicaragua la primera a mediados del siglo diecinueve cuando el mercenario walker intento crear una extensión de estados unidos en centroamérica a comienzos del siglo veinte

los hizo morder el polvo de la derrota y los expulso del territorio nacional y en el setenta y nueve cuando hicieron huir a anastasio

asegura que cuatrocientos cuarenta y ocho personas fallecieron desde que comenzaron las protestas mientras que la comisión interamericana de derechos humanos calcula que son

en nicaragua son lamentables los opinadores hegemónicos invisibilizaron también la crueldad y el salvajismo de algunas protestas

incendiaron escuelas dejaron militantes mientras tanto

se obvió la dura y brutal represión del gobierno ikerketa eskatzen diogu gobernuari

esku hartzerik ez berriz ere errepikatzen dugu pero los errores que se han cometido los desvíos de la senda revolucionaria

los tendrá que superar el propio pueblo nicaragüense sin injerencias llegadas desde washington vía luis almagro y la organización de estados americanos

las negociaciones permitirían evitar la transformación de la revuelta actual en una confrontación mayor y no queremos eso con una terrible secuela de víctimas y nefastas consecuencias

una solución pacífica en nicaragua es el mejor camino para evitar la peligrosa utilización imperial del conflicto la única solución es girar hacia la izquierda emprender un nuevo ciclo revolucionario mediante reformas políticas

al campesinado que reconozcan los derechos plenos de las mujeres y de los pueblos originarios y que restablezcan un estado laico democrático socialista y popular patria libre o morir decían los sandinistas

presidenta señorías la historia de los nicaragüenses del último siglo es realmente una historia dura y cruel es una historia en la que primero tuvieron que hacer frente

de los estados unidos después tuvieron que soportar durante varias décadas una dictadura y finalmente

parecía que en nicaragua se habría un escenario

de avance de cohesión social y las cosas que todos anhelamos para las sociedades libres y para las sociedades democráticas

tenía una enorme simpatía en la izquierda internacional y prácticamente en todos los progresistas y en todas las gentes que amaban

para que nicaragua fuera otro país fuera

y no fuera un país de la corrupción de la dictadura y del asesinato y hay que decir que hubo un primer periodo de ese gobierno liderado

avanzó avanzó en la sanidad en la educación en la reforma agraria en la igualdad de género hubo un periodo importante de crecimiento económico y de reparto

de los recursos que tenía ese país yo creo que eso es innegable y es innegable que precisamente por lo que ha vivido nicaragua por tener que quitarse la ocupación de los estados unidos de encima por tener que derrocar a un dictador y por haber hecho después un periodo democrático en el que hizo

es innegable que los nicaragüenses son capaces y son suficientes para resolver sus problemas y que además deben ser los que los resuelvan

deben ser los que traten de resolver sus problemas ahora bien cuando una manifestación celebrada hace unos meses acaba con

yo creo que aquí ya no hay un problema nacional de nicaragua y un problema solo de los nicaragüenses creo que hay un problema internacional porque

y queremos pertenecer existe lo que se llama la defensa universal de los derechos humanos

existe el compromiso generalizado y por eso participamos en cantidad de lugares de plataformas de organismos en los que tratamos de velar por ese tipo de comportamientos a nivel general

por eso queremos desde europa muchas veces mediar ante situaciones de estas características que se dan en diferentes lugares del mundo y por eso este parlamento muchas veces se pronuncia internacionalmente en lugares donde podríamos decir el parlamento vasco no dice nada porque ya son suficientes

una ayuda internacional que pueda haber una ayuda solidaria y este parlamento se quiere pronunciar porque tiene

y porque aquí también lo tiene que hacer en nicaragua en estos momentos hay una coincidencia internacional de todas las plataformas y de todos los responsables de la información es decir de los profesionales de la información

en nicaragua es una evidencia que ha habido una vulneración constitucional porque hay una limitación de mandatos

perpetuarse en el poder en nicaragua hay muchas cosas que se están haciendo mal y que nosotros podemos hacerlo

podemos criticarlo con un espíritu absolutamente solidario con los nicaragüenses y además por supuesto dándoles el apoyo para que sean ellos los que resuelvan los problemas ahora cuando en una manifestación por una oposición a la reforma de la seguridad social

y hay esa situación que sale al mundo y que la saca todo el mundo además que es que no es algo que está dirigido por oportunistas o por gentes de dudoso proceder que se suben al carro que también los hay sino que todo el mundo se ha posicionado

un posicionamiento unitario un posicionamiento en el que se han apreciado y se han investigado sobre todo los aspectos que en estos momentos están ocurriendo en nicaragua y tiene una declaración una resolución donde los cita y dice todo lo que se ha visto

a favor de la defensa de los derechos humanos a favor de que en nicaragua se replantee una situación de democracia y sobre todo de libertad de reunión de libertad de expresión de libertad de información

como se ha dicho aquí nicaragua es un país en estos momentos enormemente empobrecido y eso nos afecta también a nosotros porque somos parte de esa liberación que hubo

solidaridad de nuestro país y de muchas gentes de nuestro país y obviamente todos queremos que

problemas donde es muy difícil atenderlos y resolverlos

hay una desigualdad enorme entre quienes tienen los ejércitos quienes tienen las armas

tan brutal como se actúo en esa manifestación y los que están planteando posiciones políticas a pecho descubierto nosotros

empezamos diciendo que condenamos absolutamente todas las muertes porque efectivamente no hay muertos de primera ni de segunda y la violencia

aconsejable ni es una solución absolutamente para nadie y no es un recurso al que desde una concepción profundamente democrática

solamente apelan a eso cuando les interesa y otras veces son mucho más suaves más livianos y más benévolos con

podemos defender con toda normalidad y con toda vehemencia que en nicaragua hay una solidaridad expresa

la población nicaragüense pero también hay una denuncia de cuál es esa situación de violencia que allí se ha creado y de falta de respeto a los derechos humanos nicaragua

porque los estudiantes se reúnen para defender sus propuestas sus reivindicaciones su visión política de nicaragua que tienen perfecto derecho a hacerlo

y eso es lo que ha llevado a este parlamento con la propuesta del partido popular de carmelo la iniciativa ha sido de él pero

y lleva a este parlamento a posicionarse y que este parlamento se posicione a favor de una mediación internacional de que una serie de observadores y de organismos puedan tratar de ayudar de mediar para que la situación se resuelva esto es algo que lo hacemos constantemente en otros lugares por desgracia

un planteamiento de hostilidad ni un planteamiento de

nadie en nicaragua sino un planteamiento de ir a favor de que se resuelva y a veces duele hacer este tipo de intervenciones porque

aquí vinieron muchos ciudadanos a vitoria también que entonces formaban parte

con los que estuvimos con los que también trasladamos la solidaridad allí cuando estaban ya en esos tiempos previos

mucha admiración incluso por las cosas que han hecho en circunstancias tan adversas los nicaragüenses pero todo eso no puede tapar o no puede

en relación a lo que está pasando es muy grave lo que está pasando y por lo tanto la comunidad internacional la comunidad democrática internacional la comunidad que defiende la defensa de la libertad y que defiende la universalización de los derechos humanos

se tiene que comunicar se tiene que pronunciar y nosotros hacemos ese pronunciamiento lo hacemos así lo hacemos con esa enmienda y yo creo que ahí caben todos los grupos de esta cámara pero bueno que cada uno

europak egin duen salaketa gurea egiten dugu cerca de cuatrocientos fallecidos alrededor

más de doscientos personas encarceladas familias destrozadas a esta dolorosa realidad hay que añadirle según responsables del sector turístico del país la pérdida de alrededor de setenta mil puestos de trabajo este sector genera unos ciento veinte mil empleos

más de la mitad pérdidas materiales a las que hay que añadirles las más graves las pérdidas humanas entre las que hay muchos y muchas jóvenes

por intentos de reforma de la seguridad social han creado la crisis social y política más grave de nicaragua desde el año mil novecientos ochenta también con daniel ortega

entre los muertos también hay menores toda esta violencia

de las protestas lideradas por los y las estudiantes a pesar de que la reforma solo quedó en un intento las protestas han continuado en los últimos meses la mayor parte de los fallecidos son manifestantes entre ellos jóvenes estudiantes los llamamientos internacionales son numerosos

ocurridos en managua y también en otros diversos puntos de nicaragua violencia y vulneración de derechos humanos por parte de los aparatos policiales y grupos armados afines al gobierno la población pide libertad y reclama derechos y nuevas elecciones

y de que por encima de nuestras diferencias políticas pesa en primer lugar el compromiso que tenemos de sacar a nicaragua de la pobreza dialogando

la unión europea suspende la cooperación policial con nicaragua por la represión

despido masivo en las aulas rebeldes de nicaragua ortega exige a costa rica una lista de nicaragüenses que piden asilo

la nicaragua de daniel ortega una democracia que se transforma en farsa

destacamos la importancia de la restauración del denominado diálogo nacional con la alianza cívica y mediación de la conferencia episcopal nicaragüense

y social es necesario iniciar una etapa de reconciliación y convivencia en el país guzti hau

alusión efectivamente hablaba el señor martínez zatón de esperanzas esperanzas cuando volvió a ganar

son esperanzas rotas son esperanzas rotas eso se ha demostrado y a veces es decir

hasta en cuestiones como esta que todos conocemos y que todos hemos visto y tratamos de verlas con equilibrio y con

que hay gobiernos que vulneran los derechos humanos sistemáticamente que son dictaduras duras auténticas dictaduras aunque antes fueron revolucionarios o

dictaduras y hay que desviar la atención hay que desviar la atención porque hay que hablar de la iglesia católica la iglesia católica que hoy es la que está con los pobres en nicaragua la que está con los pobres y está sufriendo precisamente la amenaza la represión y la

derecha internacional sin ningún género de dudas mire hoy hay una pobreza estructural y hay en muchos países

pero esos problemas se han agravado con la presencia

y yo creo que en relación con alguna de las alusiones que hacía a la proposición no de ley y a nuestro escoramiento usted no ha leído bien la proposición

es decir lea la palabra todos en el primer punto es claro el parlamento vasco condena todos los hechos de violencia acaecidos en los últimos meses en nicaragua les decíamos que la necesidad de que se respeten los derechos humanos de manifestación de reunión de libertad de expresión así como que se

todas las muertes acaecidas en la crisis

usted tiene que dar la razón que nosotros hablábamos de todos pero poníamos el acento donde ha estado la violencia y donde se está convirtiendo en violencia y en represión

lo que dicen los que son declaraciones de organismos o de organizaciones internacionales oiga las organizaciones internacionales o los organismos la oea

de lo que hablan en primer lugar en sus declaraciones es de condenar los crímenes y los asesinatos y de condenar la actuación

en todos ellos del diálogo nacional y de restablecerlo y de que pueda haber y de que se modifiquen los comportamientos también habla de esas cuestiones y nosotros además hemos hecho esta iniciativa pues porque también nos la pidieron

que nos explicaron con objetividad esa realidad nosotros la hemos contrastado conjuntamente con otras instancias con la unión europea la

una entelequia o la preside un señor con el que yo tampoco estoy de acuerdo en las cosas que pueda decir la presiden y la

importantes y que están ahí y que desde luego analizan su entorno de una manera clara y realista la señora etxebarrieta ha hablado de

escuchar sobre nicaragua ha dicho más es doloroso y triste y eso desde luego es lo que nos manifestaron los estudiantes que vinieron a la cámara en junio eso es lo que nos manifestaron que es triste y doloroso lo que

y desde luego empezando por el régimen y la represión institucional la derecha internacional estados unidos ese no es el problema de nicaragua de nuevo una revolución hubo una revolución

que triunfó también estaba entonces la derecha internacional y también estaba estados unidos ahora

un proceso de involución protagonizado por alguien que no supo administrar el supuesto éxito de la revolución y se convirtió en la sombra

de cintura en un debate como este pero yo creo que le amarran todavía algunas consideraciones ideológicas y políticas de las que será bueno que se

que cuando siga avanzando siga siendo igual de comunista que cuando empezó a caerse de mi cabeza centrémonos en lo que hemos venido a debatir pero sí que

y no hablamos del actual gobierno pero es que cuando hablamos de la historia creo que hay que ser un poco rigurosos es decir ganó la revolución sandinista y luego

igual la contra miles millónes de dólares de financiación

y la triunfante revolución nicaragüense igual algo tiene que ver

con que la guerra estuviera en una situación bastante dantesca y con que al final se hiciera un pacto para hacer unas elecciones que al final el frente sandinista perdió y aceptó la derrota quizás la contra y el papel de estados unidos tuvo algo que ver quizás no lo sé la historia juzgará

de pobreza estructural en nicaragua claro y en todo centroamérica y en toda américa latina se llama capitalismo se llama un comercio

los flujos comerciales que tenemos entre el norte y el sur que oprimen a los países

en américa latina y en el sur que administran este tipo de situaciones que el capitalismo lo que hace es ahogar

los sueños de justicia social de los pueblos en este caso de américa

la jerarquía católica está a años luz

de base de la iglesia católica porque creo que estar en contra del derecho

del pueblo y lo mismo que he criticado que el gobierno no legalice el aborto critico que la iglesia haga campaña

la iglesia católica y el conjunto de las iglesias y sí crítico y seguiré criticando

en su transacción a la oea como un elemento

les va bien una intervención militar yo creo que con esos mediadores no hacen falta

y vuelvo a decir no en su texto literal no hay una condena explícita a la violencia de un sector de la oposición es muy genérica

también del debate que se dio en el parlamento europeo y de la aportación de la izquierda unitaria europea izquierda verde nórdica en ese debate de una condena la violencia que se ha sufrido en la crisis de nicaragua a toda a la que se ha producido por parte de la policía y también a los sectores de la oposición

no le he escuchado en ningún momento hacer referencia a casas de escuelas quemadas

en plena calle etcétera etcétera la represión y la violencia es condenable siempre y todas las muertes son condenables y todas hay que investigarlas y tenemos que acabar con esa violencia y lo único

ohiana etxebarrieta desde el mayor de los respetos a la madurez del pueblo de nicaragua lo único que le recomendamos y que nos ponemos a su servicio es para fomentar el diálogo

y la paz y sobre todo la no injerencia insisto hacer apelaciones

jamás por tanto no vamos a votar su iniciativa

seguimos defendiendo esa condena a toda violencia que se investiguen todas las muertes que haya un diálogo nacional y haya paz en nicaragua que es lo que quieren todos y todas las nicaragüenses y que no haya injerencias en los asuntos internos en nicaragua eskerrik asko

que su propuesta suavecita y que dejan pasar no sé si se hacía referencia

a la enmienda que habíamos hecho nosotras pero me gustaría saber de suavecita qué tiene

aquí no hay crítica a la violencia que también ejerce el gobierno si no hay una crítica a la participación que ha tenido

la negociación y se vuelve a pedir que se ponga en marcha la mesa de negociación donde tiene que estar el gobierno tiene que tomar sus decisiones tiene que hacer sus pasos

por las diferentes y legitimas propuestas que ha estado llevando a la calle hasta ahora beraz

decía el señor martínez zatón que su propuesta estaba inspirada en la unión europea en la declaración de la unión europea y además

planteaba que había una serie de cosas sobre las que no nos pronunciábamos

bien yo creo que a veces leer con detenimiento las iniciativas es bueno

dice exactamente por último el parlamento hace suyos los pronunciamientos de las instituciones de la unión europea

ya estamos asumiendo todos los planteamientos políticos que se hace en la resolución de la unión europea del dieciocho de mayo se habla de que las autoridades nicaragüenses pongan fin a los actos de violencia y también se habla se pida a los manifestantes y a las organizaciones de la sociedad civil que están al frente de las protestas que se abstengan de recurrir a la violencia

que en esta declaración se insta a las autoridades nicaragüenses a que presten a los agentes de la sociedad incluidas las fuerzas de la oposición a los periodistas y a los defensores de los derechos

activistas en defensa del medio ambiente y la sociedad civil espacio suficiente para actuar libremente

esto es lo que se está planteando a estos elementos concretos

es decir que nosotros hablamos de condenar todo tipo de violencia

hablamos de recuperar los derechos democráticos de defender todos los derechos humanos todo esto está en esta declaración sin embargo

no dice absolutamente nada de esto es decir usted pasa de puntillas por todas estas cosas usted no habla de la

en estos momentos no existe allí y que está reconocida internacionalmente

vulnerando lo establecido en la constitución de nicaragua

en cuanto a los mandatos que están tasados y que no pueden prolongarse no habla de la corrupción que en estos momentos es

en relación a algunas de las familias en el poder no habla de los vetos a los observadores que se están planteando cuando luego aquí queremos ser observadores en medio mundo es decir de esto pasa de puntillas por eso suavecita

pero por supuesto que nosotros nos hemos pronunciado

sobre todos y sobre muchos más que están en esta declaración

unitaria muy medida investigada muy documentada

porque probablemente iban a encontrar otra nicaragua que la que a ustedes les llegan no se sabe por qué tipo de agencias de información ahora bien

estoy de acuerdo dicho todo esto con que nicaragua además de estos problemas que ahora mismo existen

de ocupación de intervención de los poderes financieros

es decir nicaragua y otro países de centroamérica y otros países de otros continentes también la desgracia de la desigualdad obviamente la desigualdad que existe en el mundo

y no el único ahora bien que todo eso sea así y que se pueda plantear no puede evitar no debe evitar y no puede ocultar

una situación de emergencia una situación de vulneración de los derechos humanos una manifestación contra la reforma de la seguridad social

heridos y con cuatrocientos encarcelados es un problema de emergencia internacional y la comunidad internacional tiene que pronunciarse y tiene que hacerlo sin tibieza